señora presidenta señora ubera no sé si el ejemplo de su compañera parlamentaria o su compañero parlamentario es el más adecuado porque efectivamente

va a tener acceso a la posibilidad de becas pero lo que tenemos que conseguir

para aquellas familias que lo necesitan se plantea una propuesta concreta para revisar las cuotas que las familias pagan en el consorcio haurreskolak creemos que yo creo que excesivamente concreta porque plantean ya y nos traen

los nuevos tramos de renta que fijen esas cuotas y que además incluye la gratuidad por

efectivamente creemos y lo hemos defendido aquí y en debates anteriores creemos que el ciclo cero tres tiene que avanzar hacia la gratuidad pero debemos

que cumpla los objetivos fijados seguimos apostando por su carácter educativo pero también cumple otros objetivos

la vida laboral y familiar y lo que tenemos que tratar es de asumir cuál es la realidad actual efectivamente el esfuerzo que hacen las familias

a planes de ayuda a esas familias es una realidad que las precuotas o las cuotas a abonar en las escuelas

para todas las familias no solo para aquellas familias que

o menos la crisis y si estamos perdiendo familias que pertenecen o pertenecían a las clases medias oiga tenemos que pensar

el esfuerzo de la administración pública tiene que tratar en este caso de apoyar a todas las familias en todos los tramos y por eso nosotros hemos presentado una enmienda que trata de buscar apoyar más a quien más lo necesita pero efectivamente buscar una progresividad que trate también de apoyar

adinerada a la que efectivamente pues no le cuesta ningún trabajo abonar doscientos euros por un hijo o por una hija en una

creo que tenemos que pensar también en los tramos medios de renta tenemos que pensar que efectivamente seguramente hay que ayudar

tratemos de ver exactamente cómo podemos ayudar a los tramos bajos pero también de alguna manera tenemos que pensar en medidas

apoyar también el esfuerzo que hacen las familias en los tramos medios de renta necesitamos apoyar a las clases medias y por eso nosotros menos es nada hemos firmado una transacción con el pnv y con los socialistas para tratar efectivamente de valorar las modificaciones que se aplican en el curso quince dieciséis ver si efectivamente

mejora la situación de aquellas familias que veían limitada la posibilidad de acceder al consorcio haurreskolak a las escuelas pertenecientes a ese consorcio a partir de ese estudio y de ese análisis incorporar mejoras para que efectivamente no solo las rentas por debajo de los diez mil euros nosotros interpretamos que tenemos que buscar también mejoras a los tramos medios de renta creemos que

otra vez extendiendo la batalla entre la pública y la privada al ciclo cero tres

a que el esfuerzo de la administración y el esfuerzo de todos avanzar hacia la gratuidad en el ciclo cero tres en los próximos años

que tenemos que dar una respuesta no solo a las escuelas del que pertenecen al consorcio haurreskolak sino también a las escuelas infantiles y también a las escuelas concertadas donde muchas familias

uso de su derecho a elegir la educación que quieren

de enseñanza que es una conquista social que yo creo que tenemos que seguir defendiendo

las políticas de apoyo a las familias en ese ciclo cero tres de manera conjunta sin hacer barreras ni distinciones entre

tiene una responsabilidad mayor con un consorcio del que responde directamente como es el consorcio haurreskolak pero efectivamente lo que hagamos a partir de aquí

definitiva para tratar de ver cómo abordan también la rebaja de cuotas en todos los tramos las escuelas infantiles municipales y también las aulas concertadas nosotros entendemos que la transacción es un paso en ese sentido para tratar de responder al esfuerzo que hacen las familias por escolarizar a sus hijos yo creo que hacer demagogia hablar de

sistema y modelo clasista cuando se ha tratado de extender desde hace ya muchos años de generalizar la educación cero tres años a la mayor parte

en los núcleos rurales también como un elemento de cohesión social pues me parece que es sacar los pies del tiesto yo creo que podemos abordar este debate de manera responsable

un proceso que tiene que tratar de ayudar a todas y a todos a todas las familias y pensar especialmente no solo en cómo garantizamos

cómo conseguimos abaratar las cuotas a las familias que están entre los diez mil y los veinte mil euros y nosotros creemos que hay que abordar un tramo entre veinte mil y treinta mil euros

señor ubera en mi defensa de la escuela pública

en este debate como tampoco la suya está en cuestión cuando hablamos de lenguas la educación temprana

a la etapa cero seis años que es una etapa como todos conocemos voluntaria no es obligatoria

uno de los buenos indicadores de la educación vasca de nuestro sistema educativo nosotros ofertamos cien por ciento de plazas

relevante y desde luego de los cuatro meses a los dos años esta comunidad viene ofertando prácticamente toda la demanda que tiene

otras familias prefieren quedarse con el bebé el tiempo que pueden hasta los dos años

del grupo familiar por tanto esta es una de las cuestiones que han supuesto un esfuerzo consolidado

y de los distintos departamentos de educación fue

arrancó con la fórmula haurreskolak otros pensábamos y seguimos a lo mejor pensando que en muchos lugares era la escuela pública la que debiera haber dado cobijo

pero ella arrancó con la haurreskolak primero en zonas rurales como sabemos y estableció un sistema un procedimiento

el municipio y el departamento de educación de tal manera que el municipio ponía las instalaciones y el departamento de educación venía a poner todo lo demás

todos yo recuerdo en mi legislatura pudimos proveer

abrimos cincuenta y uno nuevas haurreskolak y dimos aproximadamente ofrecimos más de dos mil plazas en ese entonces hoy

una bajada de natalidad esta es una malísima noticia para la sociedad vasca para nuestra sostenibilidad pero es lo cierto que tenemos menos niños menos niños y eso puede dar también

de por qué el consorcio haurreskolak no tiene la misma

la señora ubera que viene manteniendo una preocupación

hizo una propuesta en dos mil catorce en la comisión de educación en la que se instaba entre otras cosas

en temas de progresividad en base a los ingresos de las familias y de los horarios por tanto hasta entonces teníamos becas y ella

que se establezcan tramos de progresividad en base

aprobamos esta propuesta con los votos de mi fuerza política del partido popular y con la abstención del partido nacionalista vasco pero el partido nacionalista vasco el gobierno cumplió esta propuesta

no parece que de manera satisfactoria parece que no de manera satisfactoria pero el gobierno incorporó a partir del curso dos mil quince dos mil dieciséis una propuesta hizo una propuesta

y la activó de progresividad con unos criterios de renta sostenible

un coeficiente de equivalencia y estableció tres tramos de rentas sostenibles de progresividad y por lo tanto de pagos a haurreskolak nadie piense nadie pensamos

muy asequible muy barato el dar atención

es carísimo pero claro las categorías de caro o barato son muy subjetivas

cuando uno tiene que hacer la comparativa y el gobierno tiene que hacer forzosamente la comparativa con lo que vale una plaza escolar en primaria en secundaria en infantil o en universidad sabe le consta

el caso es que efectivamente el gobierno establece unos nuevos precios públicos del consorcio haurreskolak y establece tres tramos

la renta estandarizada me refiero y por lo tanto el precio sería

euros para cuotas de ocho horas y noventa y cinco para cinco horas y

doscientos ocho y ciento sesenta euros esto es lo que hace el gobierno y lo pone en marcha

hay una cuestión que es importante y que yo creo que toda sociedad debe acostumbrarse a hacer lo que no se puede es plantear procedimientos

esto hay que evaluarlo hay que evaluar el impacto económico y social que tal medida tiene

porque hemos pasado nada menos y nada más que de un sistema de cuotas y becas a un sistema de cuotas y bonificaciones

puede traer alguna ventaja a la familia porque la beca se recibe en un momento determinado

y es muy importante cuando se trata de becas no solamente hablar de cuantías

y esto es un sistema de bonificaciones que puede recibir la familia en el mismo momento que se presenta para el servicio

y tiene la bonificación por lo tanto a priori tiene alguna ventaja aparente pero no sabemos por lo menos

si esta medida tiene un impacto social y económico que es el que se pretendía y cuál es el que se pretendía oiga el que se pretendía es

más desfavorecidas puedan sin embargo acercarse al servicio que se puedan acercar al servicio eso es lo que pretende la proponente pero lo que pretende la proponente

es decir exactamente cuánto está favoreciendo esto a las clases más desfavorecidas por lo tanto lo que nosotros proponemos hoy aquí los que hemos pactado las medidas oiga estamos hablando de una medida

se acaba de poner en marcha luego no es momento de cambiar

de aplicar esta medida por lo menos tengamos año y medio de perspectiva

que no da resultado entonces hay que ir a mejorar máxime si efectivamente como el gobierno ha anunciado en alguna ocasión que va a dedicar décimo millónes de euros a la educación infantil o a la infancia

pues si va a dedicar décimo millónes de euros a la infancia este es un buen sitio

por tanto la pretensión de la enmienda transaccional

aquí tenemos una propuesta implantada por el gobierno hace prácticamente dos días

una revisión de la propuesta conozcamos su impacto social y económico y efectivamente creyendo en la buena fe del gobierno y en la buena fe y la confianza en que el gobierno también quiere

de las personas que peor lo pasan hagamos que el gobierno una vez evaluada la medida aporte precisamente a las personas que están en peor situación una oportunidad

buenas tardes compartimos los argumentos expuestos o muchos de los argumentos expuestos por los diferentes grupos y compartimos también los argumentos expuestos por el grupo proponente en su

más allá de exageraciones y demagogias varias que en todos los debates suelen plantearse por parte de los diferentes grupos podemos decir que compartimos la filosofía general de lo que el grupo proponente propone el asunto digamos no sé si el problema es que

eh bildu propone digamos una propuesta cerrada propone cuatro tramos concretos una propuesta muy cerrada y concreta pero que en todo caso podría servir como

y que en todo caso también supone una modificación del cuadro puesto en marcha por el gobierno vasco y del que se evidencia también una filosofía avanzar hacia la gratuidad y avanzar hacia la progresividad y por lo tanto propone una modificación concreta en relación a lo que está haciendo el gobierno vasco

del gobierno vasco y pensamos en nuestra opinión que debería modificarse pensamos que tiene que avanzarse en lo que se refiere a la progresividad teniendo como objetivo no sé si en el corto pero al menos en el medio plazo la gratuidad en el tramos de cero a tres años este creo que debería ser

me llama la atención que ahora lo que se proponga por parte de los grupos que han firmado la transaccional sea evaluar lo que se acaba de poner en marcha yo creo que antes de poner en marcha una decisión política una propuesta lo que hay que tener en cuenta

sino cada cuánto tiempo tiene que evaluar el gobierno vasco sus actuaciones y en concreto

haya un grupo parlamentario que plantee el debate en este parlamento

de evaluar lo que se ha hecho y los resultados obtenidos por las decisiones tomadas y aplicables para este curso estas son digamos un poco las dudas que me surgen

el acuerdo sobre la adaptación de los criterios de matriculación del consorcio haurreskolak aprobado en la comisión de educación el dieciocho de junio de dos mil catorce que creo que no ha sido totalmente cumplido no al menos en toda su

este seria yo creo lo primero que este parlamento debería hacer y recordar instarle al gobierno al cumplimiento escrupuloso de un determinado mandato parlamentario por otro lado proponemos instar al gobierno vasco a presentar en el plazo de tres meses un informe socio económico sobre las familias susceptibles de hacer uso de los servicios de haurreskolak con el fin de definir tanto los tramos horarios como los tramos económicos del modo más correcto posible garantizando el acceso real a este servicio y finalmente lo que hacemos en el último punto es instar al gobierno a diseñar un plan para la implantación progresiva de la gratuidad

por todos los grupos y mientras no puede o podemos llegar a ese objetivo tratar de mejorar los criterios de progresividad ya puestos en marcha porque es cierto que se han puesto en marcha criterios de progresividad pero creo que esos criterios de progresividad

mejorables y efectivamente a las familias con rentas bajas o medias pues yo creo que se les perjudica y por lo tanto ahí habría un margen también

la necesidad de diseñar un plan para la implantación progresiva de la gratuidad en el tramo de cero a tres años por lo que se refiere a la transaccional

tomada cada cuánto tiempo va a tomar el gobierno esta

yo creo que en todo caso es una transaccional para salir del paso que no dice demasiado y que no va a servir para nada que se queda corta y que es muy poco ambiciosa y por esto nosotros mantenemos nuestra enmienda de totalidad que es mucho más exigente

prestando a las familias un servicio asistencial mediante el cuidado y atención a los menores de dos años para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral

desarrollando íntegramente la personalidad reforzando los valores la actitud y los conocimientos para integrarse responsablemente en la sociedad

impulsando las condiciones idóneas que tengan en cuenta las dos lenguas oficiales en euskadi garantizando e impulsando en las haurreskolak el euskera como lengua laboral y también de servicio

como decía se ha implementado este curso dos mil quince barra dos mil dieciséis un nuevo sistema de cuotas

el nuevo sistema reduce las cuotas mensuales en dos de los tres tramos

implementando también una reducción de la prematrícula de ciento cuarenta y ocho a noventa y uno euros

un sistema más equitativo para las familias usuarias permitiendo escalonar el esfuerzo económico que realizan en base a su nivel de renta

por tanto de abonar todas las familias una misma cantidad

se ha pasado a abonar la cuota divida en tres tramos diferentes teniendo en cuenta la renta estandarizada

en qué consiste esta división de tramos de menos de diez mil entre diez

siempre hablando de renta estandarizada qué significa esto pues que el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar

a cada una de las personas que componen la unidad familiar del que corresponde de diferentes coeficientes no voy a ponerme a explicaros ahora qué tipo de coeficientes son

hijos integrantes hijas integrantes y demás queda recogido y explicado en el acuerdo

este es un sistema basado en la renta estandarizada lo recoge la ley trece barra dos mil ocho de doce de diciembre de apoyo a las familias sobre las escuelas infantiles

con el fin de dar un trato más equitativo a los distintos tipos y situaciones familiares y por qué explico todo esto pues porque los tramos que han surgido de este nuevo sistema

basándose en tramos de progresividad en base a ingresos de las familias y de los horarios horixe bera esaten zuen bere prentsa aurrekoan eta

no todos los años efectivamente solamente si fuera necesario hori da berrikuspen bat egin diezaion jaurlaritzak beti ere

el que menos tiene más paga estilo pnv psoe estilo

voy a explicar los motivos por los que el grupo socialistas vascos ha presentado esta iniciativa

también como podrán comprobar ustedes en la exposición de motivos la circular del treinta de diciembre del dos mil ocho entre otras pensiones estaba

con una discapacidad reconocida igual o superior al sesenta y cinco por ciento mayor de veintitrés años solo cuando la persona era titular de la prestación en el dos mil diez el decreto ciento cuarenta y siete que regula la renta de garantía de ingresos ya en su artículo cinco punto cuatro

nuevos supuestos de unidad de convivencia atendiendo a la evolución social y en particular a la evolución de los modelos familiares la consideración

con todas las consecuencias que conlleva no solo económicas sino también

pasa por la inserción laboral y cumplirá la convicción sobre los derechos de las personas con discapacidad y el resto de la normativa que se desarrolla así como con los compromisos asumidos en la estrategia europea sobre la discapacidad

lanbide aprobó el treinta de mayo del dos mil once una circular que modificaba la anterior en la relación con la figura de prestación por hijo hija a cargo con una discapacidad reconocida igual o superior al sesenta y cinco por ciento

como si no lo es por estar legalmente incapacitado arratsalde on señor consejero ambos casos serían considerados pensionistas

especial a efectos de la renta de garantía de ingresos criterio que era compartido por lanbide y digo que a efectos de la renta de garantía de ingresos en dos mil catorce lanbide vuelve a cambiar el criterio comenzando a considerar únicamente como unidad de convivencia de pensionistas a los perceptores de la prestación por hijo a cargo en el caso de que sean huérfanos de padre y madre aunque convivan con hermanos sí

tanto cuando son titulares de la prestación como cuando no lo son por estar legalmente incapacitados

de la prestación no les considera que tengan el derecho al denominado complemento de pensiones por entender que no están comprendidos precisamente en ese artículo nueve punto dos

para la garantía de ingresos y la inclusión social lanbide fija su atención en la titularidad y no en quién es la persona beneficiaria y destinataria

que la persona causante es siempre quien tiene la discapacidad y que la persona titular beneficiaria es el o la progenitor o progenitora a quien teniendo a su cargo a su hijo o hija con discapacidad la seguridad social le concede la prestación

la titularidad de la prestación se traslada directamente al hijo o hija con discapacidad en este momento es cuando la persona causante de la prestación es también la titular de la misma me parece importante explicarlo así lanbide empieza a comunicar

a las personas que con anterioridad les había reconocido esa prestación y ahí está la clave de todo esto

prestaciones económicas recibidas lo que estamos denominando pagos indebidos sé que lanbide de momento ha paralizado esta cuestión o por lo menos son las noticias que me están llegando

esta carta me la ha hecho llegar al correo electrónico de mi parlamento hablo en nombre de mi hijo de quien soy madre bueno el parlamento no es mío digo el correo del parlamento disculparme ha sido un lapsus

en defensa de los derechos de su hijo hablo en nombre de mi hijo

mi hijo es una persona con discapacidad psíquica del sesenta y ocho por ciento incapacitado judicialmente y reconocido por el gobierno vasco como unidad familiar independiente desde mayo del dos mil once

en junio de dos mil trece tal y como establece la ley y el decreto regulador de la renta de garantías solicito la renovación de la renta de garantías

sobre mi hijo que se entrego me relaciona los documentos pero me los voy a ahorrar

sus aitas y tutores que entregamos documentos entregados por segunda vez ya que se habían entregado en la documentación inicial

denegando la prestación que hasta la fecha había estado cobrando por falta de documentación

y que podíamos hacer nos decían un recurso potestativo o recurrir a los tribunales teníamos dos meses de plazo para cualquiera de las dos opciones

reposición al señor director general de lanbide la documentación era exhaustiva detallada y ampliada

como tardaban en contestar dice reclamamos a finales del dos mil catorce un año después y aportábamos más documentación la circular

en esta situación a ser consideradas unidades familiares independientes y la respuesta a la pregunta sobre este tema en el parlamento vasco de diciembre de dos mil catorce que entonces

diciendo que la aportación de documentos relativa a su hijo no se produjo en tiempo

que han presentado reclamaciones en el ararteko en agosto de dos mil trece

que hay muchas personas que han presentado quejas en la oficina del ararteko y por lo tanto recurre a nosotros

después de tanto tiempo porque el grupo socialista ha preguntado al departamento y hemos estado indagando y nos han estado llegando expedientes sobre esta cuestión hemos

que no está actuando bien lanbide en esta cuestión porque la ley del dos mil ocho de la renta de garantía de ingresos es la que prevalece y el gobierno no puede cambiar un criterio ante una ley tendría que cambiar una ley para que el gobierno cambiará un criterio yo entiendo que esto es así

por eso hemos registrado esta iniciativa y no hemos hecho más que recoger la resolución del ararteko en la que insta al gobierno vasco a que defina comunidad de convivencia propia similar

a los efectos de dicha ley a las personas con dieciocho años cumplidos con un grado de discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento y que por ello sean causantes de la prestación económica familiar

como cuando no lo sean sus progenitores o bien tutores por estar legalmente incapacitados y en segundo lugar instar

en esta modalidad por no producirse ningún cambio de circunstancias desde su reconocimiento y no haber cumplido las previsiones establecidas para la revisión de los actos administrativos declarativos de derechos en el artículo ciento dos ciento seis de la ley de régimen jurídico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo común

esta persona que me ha enviado esta historia no ha podido ir a los tribunales porque entre medio desgraciadamente bueno pues es una persona que ha enfermado de cáncer pero ella dice que lo que más le duele es que

el derecho de cobrar su hijo esa prestación que ha estado cobrando dos años y el que lanbide no le haya dado ninguna respuesta

que le falta documentación que no ha entregado en tiempo y que cuando lo ha entregado todo le podía haber dado otra causa pero la causa ha sido esa

por la confidencialidad de datos yo tengo esas resoluciones y efectivamente es así me he podido cerciorar que es verdad respecto a las enmiendas que hay con respecto a

políticas sociales y desproteger a los y las ciudadanas más vulnerables de nuestra sociedad yo entiendo que evidentemente es una enmienda que ustedes han metido

en el tema que hemos traído aquí que no quiere decir que no estemos de acuerdo con que no se tiene que utilizar los desarrollos legislativos para devaluar los derechos de las personas

y en cuanto a la enmienda a la totalidad del partido nacionalista vasco pues bueno no tiene nada que ver con lo que nosotros décimos ellos instan

la interpretación de la normativa aplicable en estos casos de hijo a cargo nosotros tenemos una normativa autonómica en esa normativa autonómica nos estamos basando hemos leído las respuestas de la consejería incluso donde reconoce que existía esa circular y que estaban respetando esos criterios y de repente en dos mil catorce se ha cambiado tenemos las resoluciones del ararteko el expediente de momento

y estamos esperando a ver lo que el ararteko le vuelve a contestar a lanbide yo creo que lo que aquí se pide

y también quiero decir una cosa las personas también tienen derecho

a tener una independencia económica y a poder tener una vida independiente independientemente de que se pueda ver las cosas de una manera u otra pero aquí no estamos hablando de un patrimonio familiar

de más de un sesenta y cinco por ciento por lo tanto esta es la cuestión no me voy a enrollar más de momento es la primera intervención y bueno pues pediría el apoyo de los grupos en relación a que además es una resolución que

zurea da hitza sí gracias presidenta habíamos presentado una enmienda de totalidad que realmente tendría que haberse presentado como de adición
en todo caso vamos a votar a favor de la iniciativa original la señora sarasua con sus argumentos me ha convencido y por lo tanto votaré a favor de ella

bat datozela gaur egun erakunde biak la discrepancia surge sobre la posibilidad de compatibilizar la prestación por hijo o hija a cargo mayor de dieciocho años con una discapacidad reconocida igual

con la rgi para ello previamente

pensionistas y recordar que la competencia para dicha declaración recae única y exclusivamente en el instituto

y una vez reconocidas como pensionistas excepcionarles

comunidad de convivencia independiente en la normativa

trataremos de explicar brevemente la diferente naturaleza jurídica

o hijo a cargo es una prestación económica de carácter

a quienes tienen un hijo o hija a cargo cumpliendo ciertos requisitos prestación conceptualmente distinta de las conocidas como pensiones

basa parte de su justificación señora sarasua también lo diferencia hay un montón de excepciones con pensiones y en otro apartado totalmente diferenciado el tema de la prestación por phc la phc se dirige a ayudar económicamente a quienes tienen hijos

en el caso de discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento la prestación se dirige directamente a los padres con hijos a cargo como ayuda

también existen las pensiones no contributivas que en cambio tienen la finalidad de apoyar económicamente a las personas que no disponen del tiempo de cotización necesario

por estar afectadas por una minusvalía igual o superior al sesenta y cinco por ciento y carecer de rentas o ingresos para su subsistencia esta ayuda económica tiene carácter

no familiar y se reconoce directamente a quien cumple los requisitos exigidos no a su entorno familiar y está además condicionada a la carencia de rentas o ingresos suficientes en el nivel que establece la normativa vigente por su parte

de naturaleza económica dirigida a las personas integradas en una unidad de convivencia que no

asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión laboral y social es una prestación no individual

siempre a unidades de convivencia aunque estas pueden ser unipersonales y su finalidad es la cobertura de necesidades básicas con carácter alimenticio de todos los miembros de la unidad de convivencia es el último recurso de tipo económico disponible para evitar o paliar las situaciones de riesgo más graves

esan bezala arrazoi objektiboetan oinarrituta por otro lado también hemos de señalar que la normativa reguladora de la seguridad social es clara respecto a la prestación por hijo o hija a cargo y diferencia

el la beneficiaria de la misma la persona causante de la prestación por hijo o hija a cargo es siempre quien tiene la discapacidad como usted mencionaba señora sarasua es una ayuda que genera la persona discapacitada la causante por su condición de discapacidad que revierte en la unidad de convivencia de la que depende que depende que la que depende y forma parte el beneficiario

es el progenitor o la progenitora a quien teniendo a su cargo al hijo o hija con discapacidad la seguridad social le concede la prestación para sobrellevar

cuando fallecen ambos progenitores la titularidad de la prestación se traslada al hijo o hija con discapacidad coincidiendo

y es en este caso cuando la seguridad social le reconoce de hecho en una situación análoga a la de pensionista

de establecer quién es pensionista siendo en este caso cuando coinciden

pensionista ellas mismas las personas discapacitadas las destinatarias de la ayuda y de ahí

se les puede reconocer una renta de garantía de ingresos complementaria de pensiones con el carácter de unidad de convivencia de pensionista computando todo su patrimonio ingresos económicos no podemos olvidarnos que la rgi se dirige a cubrir necesidades básicas no económicamente a cualesquiera situaciones gravosas susceptibles de protección por parte de los poderes públicos que tendrán otros medios para reclamarse pero no desde luego

el problema surge con una circular de lanbide del año dos mil once como se mencionaba

como si no lo es por estar legalmente incapacitada y esta

es la que dio lugar a múltiples interpretaciones algunas se basaban en la segunda parte de la misma obviando la primera la que exige ser

se instaron bastantes procedimientos para incapacitar legalmente a los hijos o hijas mayores de dieciocho con discapacidad igual o superior a sesenta y cinco por ciento

gurasoak hil ondoren por lo tanto lanbide a partir de ese momento considera unidad de convivencia de pensionistas exclusivamente a dos colectivos los huérfanos que no sean titulares de la prestación por estar legalmente incapacitados y

este criterio se aplicará a partir de ahora a todas las nuevas solicitudes pero no se ha exigido la devolución de cantidad alguna motivada por este cambio de criterio

el más acorde a derecho y a la interpretación que viene haciendo la seguridad social

la iniciativa del partido socialista pretende modificar la normativa de rgi para que se pueda considerar a las personas con discapacidad como unidad de convivencia propia como pensionistas

y ello a pesar de estar cobrando la prestación por hijo a cargo

las considera pensionistas no habría ningún problema en proceder de acuerdo a la interpretación que realiza la proponente pero insistimos que es necesaria la previa declaración de pensionista

está pidiendo una modificación de la ley de forma cuando menos poco ortodoxa y que por los motivos que hemos expuesto no compartimos

aplicado actualmente por lanbide no se ha aplicado con carácter retroactivo en cuanto a la enmienda de la totalidad de upyd nada que ver con la realidad ni con el tema planteado aprovecha una vez más el señor maneiro aunque no está para hablar de recortes en políticas sociales

que repita ese argumento no se va a convertir en realidad y en este caso lanbide lo que hace

que es quien concede la prestación por hijo a cargo y reconoce la condición

muchas gracias señora presidenta señora sarasua

le diremos que vamos a votar a favor de su iniciativa pero no estamos de acuerdo con los argumentos del ararteko

si me intento explicar ya sé que a la señora arregi no le voy a convencer

pero yo creo que en este caso y en otros muchos en este parlamento se pierde a veces la noción de la realidad o de lo que en su día hicimos le digo que no comparto los argumentos porque la ley de garantías de ingresos

no es ningún complemento de pensiones de ningún tipo entonces discrepamos hasta en el título de su iniciativa

no la hicimos no la creamos no la reformamos con ustedes

para que fuera complemento de ninguna pensión o no pensión de ningún tipo y entonces de vez en cuando conviene recordar para qué aprobamos

leer el artículo uno la presente ley tiene por objeto regular el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social y en su marco el derecho a las prestaciones económicos y a los instrumentos orientados a prevenir el riesgo de exclusión

y a facilitar la inclusión de quienes carezcan de los recursos personales sociales y económicos suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos sociales de ciudadanía y esto era al margen de que se cobren o no pensiones al margen

porque era al margen de todo eso porque era unos mínimos

que tenía todo el mundo derecho y aquí para nada planteó nunca nadie en su momento si tenías que tener derecho

contributiva o no contributiva de la seguridad social yo en este artículo no he visto nada de la seguridad social para nada

un artículo de la ley de dos mil ocho que no se modificó

se modificó el artículo veintiocho que es el que dice cuando alguien que tiene derecho a una prestación reconocida se le puede quitar

el cambio de criterio de lanbide ni del gobierno ese no viene en esa ley

y lo que no entiendo y digo que no entiendo en este caso en el partido nacionalista vasco es que nos diga que sea claro la señora arregi nos dice

el gobierno vasco y el pnv coincidimos en la misma interpretación a mí la interpretación que haga la seguridad social

voy a decir que me da igual porque su competencia es cero

es plena entonces cuando llevamos una legislatura entera hablando de cómo se nos recortan cómo era

gobierno la recentralización verdad

cuando tenemos competencia exclusiva en este parlamento para decir quién tiene derecho o no tiene derecho a cobrar la renta de garantía de ingresos y jamás hablamos

que nos digan que es que tenemos que ponernos de acuerdo con la seguridad social para la interpretación alucino alucino y este es un problema que ha heredado el señor consejero del anterior consejero

del gobierno o de lanbide o de los dos juntos consultada o no la seguridad social que nos da lo mismo porque nada pinta

a la renta de garantía de ingresos tal y como la creamos y tal y como se desarrolló pero también igual como todos los grupos aquí todo el mundo hace su demagogia particular con el tema

la renta de garantía de ingresos nunca se planteó en este parlamento por ningún grupo como nada parecido nada tiene que ver

con los ingresos o no que se tienen y en este caso

estamos hablando personas con minusvalías del sesenta y cinco por ciento o más lanbide les reconocía este derecho se lo reconocía señor consejero

y saltándose el propio artículo de la ley que se reformó en el dos mil once el veintiocho se reinterpreta a sí mismo y se lo quita

no previsto en la propia ley de la renta de garantía de ingresos y además si estuviéramos hablando de un problemón que afectara a miles de personas que gracias a dios no

en fin que es que fuera suponer un problema para la gestión de lanbide esta gestión tan fantástica que a quien no le corresponde se reparten más de cien millónes y a quien le correspondía no se le da pues vuelvo a alucinar con la postura del gobierno vasco y del partido nacionalista vasco en este tema

en fin a mí se me ha acusado muchas veces en esta tribuna de ser el insensible social

social mucho mayor que la mía a todos les reconozco en este parlamento mucho mayor que la mía

que deberíamos de volver al espíritu de lo que era la ley y yo entiendo que el señor consejero esté muy orgulloso de que haya muchos inmigrantes que no han cotizado nunca ni trabajado nunca ni pagado impuestos nunca que cobren la rgi no no sí sí yo le entiendo que usted esté muy orgulloso

si los vascos con discapacidad del sesenta y cinco por ciento
que se les reconocía ese derecho también lo tuvieran eskerrik asko damborenea jauna

egon direla eta pero de una manera resumida lo que ahora está ocurriendo con el colectivo al que esta proposición no de ley se refiere lo que ocurre con las personas mayores de dieciocho años que tienen una discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento

que recibir el complemento de pensiones de la renta de garantía de ingresos y la prestación por hijo o hija a cargo que perciben sus progenitores o tutores

o hija que tenga al menos dieciocho años cumplidos eh bildu tiene muy claro que este ingreso mensual es insuficiente

al año trescientos sesenta y siete coma noventa al mes por eso consideramos que son perceptores y perceptoras

aunque también es cierto que resulta paradójico que nos tengamos que encargar de complementar una prestación que la seguridad social está realizando de una manera insuficiente

en la necesidad de tener soberanía plena para gestionar esta competencia hala ere gure esku dago gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legea

eskubidea dute y si el problema es una incompatibilidad de prestaciones

es detenerse en la finalidad de la prestación analizar su naturaleza para intentar dignificar de alguna manera una situación de discapacidad porque también

que le puede hacer falta cubrir unas necesidades básicas en este caso

delako y según consta en la justificación del grupo proponente lanbide comunica la extinción la no renovación de este complemento

y que incluso en algunos casos se ha comunicado la obligación de devolver esas prestaciones económicas recibidas previamente al cambio del criterio a pesar de que las señora

datos para posicionarnos en un lado o en el otro no tenemos datos que nos hagan pensar quién tiene la razón en este caso por tanto es vamos a entrar a discutir porque sobre todo lo que no podemos obviar y creemos que es importante en este asunto es la consecuencia de una decisión como la que se ha tomado y lo que tenemos muy claro es que

elevado de discapacidad les facilitaría tener una mayor independencia económica más autonomía mayor participación activa en la sociedad entre otros beneficios no olvidemos que lo que se percibe por phc no llega a los cuatrocientos euros y los gastos extraordinarios

ortopedias productos de apoyo entre otros son gastos muy importantes por tanto si de verdad

tenemos que poner los medios que tengamos a nuestro alcance para cumplir ese objetivo herramientas las tenemos ley de garantía de ingresos dos mil ocho en general y rgi en su modalidad de complemento de pensiones en particular

es cierto que últimamente parece que nos estamos dedicando a parchear y hacer iniciativas en torno a esta ley y en más de una ocasión también lo hemos dicho antes lo que

es sentarse a hacer una reflexión profunda completar y ampliar derechos una reflexión profunda en torno a esta ley y a la renta de garantía de ingresos en particular hala ere

de las prestaciones familiares que tiene características semejantes a otras prestaciones por invalidez contributiva o no contributiva lo que quiero decir por lo menos aquí

usted ha dicho una serie de cuestiones con las que yo desde luego no estoy de acuerdo porque hace afirmaciones pero es que sus argumentos tampoco es que la respalda porque a ver hay una circular el treinta de diciembre de dos mil ocho y luego hay un decreto

que es norma que emana de una ley por lo tanto yo creo que es un peso jurídico

unidades de convivencia en base a las necesidades sociales y económicas y así se hizo en esa circular del dos mil once

la renta de garantía complementa ingresos no complementa pensiones estoy de acuerdo con lo que

que esa prestación lo que se está concediendo es a la unidad de convivencia no a la persona individual entonces si tenemos dos unidades de convivencia

un poquito debatiendo yo pienso que estas personas que constituyen una unidad de convivencia independiente como así se lo reconocía la circular de dos mil once

también unas causas añadidas que ya lo ha explicado la representante de eh bildu y por lo tanto también pueden ser causantes y beneficiarias de la renta de garantías como un complemento de ingresos yo le quiero decir

sentido nuestra proposición de ley y no tenía fundamento jurídico alguno la sentencia ciento cincuenta y siete barra dos mil catorce de treinta y uno de marzo dice

dos mil ocho para la garantía de ingresos y para la inclusión social en su artículo veintitrés reconoce el derecho a la prestación reconocida en tanto en cuanto subsistan las causas

y se sigan cumpliendo las condiciones de acceso a la prestación por lo tanto si se mantienen las causas que se dieron lugar al reconocimiento pues

y de hecho el artículo veinticuatro permite la revisión y el control atendiendo a las

la suspensión cautelar está prevista en el artículo veintisiete de la citada ley para aquellos supuestos de

no se habilita a la administración por tanto ni a la ley autonómica ni en su reglamento ni en la ley autonómica ni en su reglamento de desarrollo aprobado por el decreto ciento cuarenta y siete barra dos mil diez para revisar los errores valorativos en aquella misma hayan podido incurrir respecto de los hechos

el cambio de criterio no puede por ello tener lugar en su caso más que a través de los procedimientos regulados en la ley treinta barra mil novecientos noventa y dos a que hemos aludido esto es de revisión de los actos administrativos que reconocen derechos esto es una sentencia firme del tribunal

de justicia superior del país vasco no cabe recurso por lo tanto si esto no es un fundamento jurídico pues bueno le indico a que la lea

y lanbide ha paralizado las reclamaciones de pagos indebidos por algo será desde luego no venimos estudiando esta iniciativa

este tema nos ha llegado al grupo socialistas desde hace ya tiempo desde el mismo momento en que empezamos a preguntarle al gobierno

habiendo detrás de todo esto y desde luego entiendo que hemos sido responsables coherentes pero es que ya hay muchas personas que están llevando sus reclamaciones al ararteko y también

desde las propias asociaciones que representan a este tipo de colectivos por lo tanto y el gobierno lo sabe que también las asociaciones les han hecho llegar su pesar por esta cuestión

al grupo nacionalistas vascos que si tiene tiempo pues bueno le dé una vuelta de tuerca a esta sentencia y

que bueno que se lo piense antes de votar eskerri asko eskerrik asko sarasua anderea

pero es cierto que en la práctica funciona como tal pero y de acuerdo a los que usted decía señora sarasua del decreto posterior de la circular de dos mil ocho etcétera si estamos de acuerdo el tema es circular es una circular que es un tema de interpretaciones

ahí cuando hace y envía habla de todas las pensiones que quedarían exentas y dice prestación por hijo a cargo o discapacitado con un grado superior al sesenta y cinco por ciento mayor de dieciocho años tanto si la persona discapacitada es la titular de la asignación

esa segunda parte es la que da lugar a los errores de interpretación porque no estamos porque titular

es en el momento cuando es huérfano así no dice el inss que será titular cuando sean

o sino cuando en ese caso cuando sean incapacitados legalmente y entonces no puedan ser titulares pero ahí también podrán cobrar la pensión la rgi además de la phc pero no cuando viven sus padres esa

que dio muchos problemas de interpretación y en las diputaciones forales empezaron a aplicarlo de una forma y de otra y de hecho en álava se bastantes procedimientos para incapacitar a los hijos basándose en esa segunda parte el tema de la incapacitación y obviando que los padres tenían que haber fallecido para poder ser titular del tema de la rgi no

la devolución de la cantidad por el cambio de criterio de lanbide no se han suspendido ni extendido de oficio estas prestaciones a quienes se les había concedido aunque naturalmente

sí se ha aplicado el nuevo criterio se recibe la

independientemente de los ingresos de la unidad de convivencia

reconoce implícitamente el esfuerzo económico que conlleva tener un hijo o hija con discapacidad igual o superior

a cargo las personas discapacitadas causantes de la

de la diputación foral correspondiente una pensión no contributiva de invalidez

no lo hacen porque la unidad de convivencia supera los límites permitidos debemos tener clara que la finalidad de la renta de garantía de ingresos es alimenticia de cobertura de necesidades básicas no

de problemática social la rgi no es una renta de emancipación ni un apoyo a la discapacidad de hecho

se pone la limitación de un año de unidad de convivencia diferenciada mediante vida independiente esto también en la propia normativa reguladora

pensión por hijo o hija a cargo se dirige a sobrellevar las cargas de la discapacidad de los hijos o hijas si se le reconociera el derecho

que disponen de cuantiosos recursos económicos con un hijo o hija discapacitado con el sesenta y cinco por ciento y a su cargo que verían a esta persona cobrando el importe

del salario mínimo interprofesional cuando en realidad tiene perfectamente cubiertas sus necesidades básicas al convivir con sus padres fallecidos los progenitores siendo causantes y titulares ya en este momento de la cuando se les puede reconocer la condición de unidad de convivencia de pensionistas con derecho

porque el legislador entiende que es en este momento cuando se encuentran en una situación económica muy distinta al no contar ya con los recursos de su padre y madre y requieren de especial protección

la seguridad social una situación análoga a la de los pensionistas en definitiva con este nuevo criterio no se quedaría desprotegida ninguna persona discapacitada porque si realmente no tienen más ingresos siempre podrían cobrar rgi

estamos ante un colectivo el de discapacidad sensible y delicado por el que las instituciones gobernadas por el pnv y este grupo parlamentario se preocupan

evitando caer en la simple demagogia eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señora blanco para una vez que tenemos soberanía plena

somos competentes la tenemos el problema no es de soberanía ese no es el problema que tenemos aquí

tenemos la misma ley desde el año dos mil ocho con esa misma ley del dos mil ocho a estas personas se les reconociese derecho y con esa misma ley el gobierno vasco cambia la interpretación

en contra de la propia ley que dice cómo se puede quitar a alguien que se le tiene reconocido el derecho y se lo he dicho antes

funciona como lo que sea la diferencia es notable porque en complemento de pensiones no tenemos competencia claro

la ley que hicimos claro por eso hicimos la ley que hicimos

en materia de bienestar social porque eso ya lo sabíamos y por eso en ningún sitio de la ley se habla de complemento de ningún tipo de pensión

y expresamente está así la ley porque sí tenemos competencia para poner una renta mínima de garantía

o si se trabaja y se tiene unos ingresos o no se tienen unos ingresos

somos nosotros nosotros dijimos nosotros aprobamos la ley nosotros aprobamos la del dos mil ocho y la del dos mil doce esa que ahora todos defienden pero

nosotros sí las dos y la de antes y por eso sabemos lo que dice y no habla de pensiones en ningún caso

yo no quería entrar en el tema este no el discapacitado con más del sesenta y cinco por ciento tiene el derecho

cuando se queda huérfano y

y cuando nos muramos los dos entonces va mi hijo con discapacidad del más del sesenta y cinco por ciento se presenta en lanbide y a lo mejor el del setenta ochenta noventa se presentan en lanbide y la pide

lo dejo ahí no voy a decir absolutamente nada porque me parece mal hacer demagogia con estos temas pero es fácil muy fácil pero para todos

olvídense de las interpretaciones de los empleados de lanbide y recuerden que el legislador somos nosotros que nosotros hemos aprobado una ley que dice lo que dice

reconocía derechos a esas personas y esa ley no se los ha quitado se los ha quitado el gobierno con una interpretación del dos mil catorce

o no porque nosotros no regulábamos eso y no regulamos eso nosotros regulamos otra cosa y por lo tanto

usted decía el legislador quiso hizo y lo ratificó

y en el doce y nadie del gobierno tendría que tener capacidad de modificar lo que el legislador

en el ocho y en el doce eskerrik asko damborenea jauna

cuando hablábamos de competencias precisamente hemos dicho que en nuestra mano esta la ley de garantía de ingresos

lo que he dicho es que resulta paradójico y ahora añado penoso que nos tengamos que encargar aquí de complementar una prestación que está dando la seguridad social que es la prestación por hijo o hija a cargo por eso decíamos que hoy más que nunca vuelve a ser necesario gestionar esa competencia

que ahora desde madrid se esta haciendo mal como queda demostrado eskerrik asko eskerrik asko

presento esta moción en nombre del grupo popular referente al sector remolachero en álava sector económico muy importante a pesar de sus sonrisas ante la desaparición de las cuotas del azúcar en la interpelación se pudo ver señorías igual que en la moción que en las enmiendas que los grupos enmendantes

que estamos en un momento de debilidad para el sector remolachero y que necesitamos un sector remolachero competente fuerte

es necesario anticiparnos es verdad que la producción de remolacha no se puede aumentar en un periodo breve de tiempo como ha pasado con la producción de leche en el sector lácteo que también ha sido afectado por una liberalización de las cuotas pero a medio plazo sí se va a producir ese aumento nos decía la señora consejera que la producción se aumentaría en diez años un cinco por ciento y que los precios

con el fin de llegar a niveles de producción que garanticen la rentabilidad del productor y la productividad de la empresa porque esto

el productor y la empresa están directamente relacionados sí la empresa no tiene producción cierra y sí el productor no tiene empresa no puede

transformadora y los productores no me voy a extender más porque se han hecho enmiendas a la moción que nosotros hemos presentado enmiendas que van muy en sintonía todas y que hemos llegado a una enmienda de transacción que voy a pasar a leerles

parlamento vasco instamos al gobierno vasco a continuar trabajando con la diputación foral de álava y las asociaciones de productores aira

que establezca en su caso líneas de actuación con el objetivo de lograr un sector remolachero competitivo estable y sostenible donde se exploren medidas ante el escenario

para el incremento de la rentabilidad en el segundo punto décimos que se articule junto con la diputación foral de álava iniciativas de formación

para el uso compartido de las maquinarias con el objetivo de mejorar la rentabilidad sectorial decimos también e instamos al gobierno vasco a que colabore con el sector para que en la medida de sus posibilidades el seguimiento

las medidas que recoge el mismo auspiciando asimismo

de modificar las medidas que supongan mejoras para la competitividad del sector que estimule el liderazgo de la diputación foral de álava y las comunidades de regantes

un sistema de intercambio de fincas con el fin de incrementar la superficie de cultivo de remolacha respetando en todo momento que se tratan de actos

y en quinto lugar décimos que se establezcan contactos con los órganos correspondientes de la junta de castilla y león al efecto de lograr acuerdos que posibiliten a fincas de una misma explotación ubicadas fuera de álava

señorías decíamos en la interpelación que hace diez años también el sector de la remolacha bueno pues ante un cambio de las directivas europeas

sufrió un importante modificación

diputación foral de álava y las organizaciones de productores se pudo llegar a un acuerdo de actuaciones que han hecho posible que hoy tengamos un sector productor potente algo tocado más débil este año va a ser un año complejo para este sector porque además de las circunstancias que rodean

alcanzar los volúmenes de superficie de siembra que todos esperábamos

y la diputación foral de álava junto con los productores trabajen en conseguir esas medidas necesarias para el apoyo a este sector y hay un grupo grupo eh bildu que ha hecho

parece que no le gustaba la enmienda de transacción yo quiero decir que la

ha sido consultada con las organizaciones de productores y matizadas con sus aportaciones por lo tanto es una enmienda que representa a la voluntad de los productores

gracias presidenta señorías buenas tardes cuando se pretende proteger nuestras explotaciones agrícolas y en este caso ayudar

los socialistas sumamos nuestros votos porque creemos en la promoción y fortalecimiento del sector

que quiere seguir creciendo y trabajando y en esa renovación imprescindible nuestra propuesta al igual que en cualquier otro sector económico pasa por políticas activas competitividad y garantías de empleo

implicación institucional coordinación e implicación social a través de campañas de apoyo al consumo de nuestros productos

la rentabilidad de este cultivo y ya de paso

porque aunque esté en una comunidad vecina de una actividad depende trabajadores y trabajadoras

los socialistas no nos ponemos nunca en hipótesis de cierres de actividad en ninguna empresa pero los riesgos de la planta mirandesa

en su área de influencia pero no podemos quedarnos solo en la defensa que hoy estamos hablando aquí debemos mirar siempre al futuro qué va a pasar sí o sí por la mayor competitividad de nuestros productos en este caso de la remolacha

y un mayor asesoramiento y coordinación técnica de las explotaciones y en esto hay que buscar la implicación de todas las instituciones forales

asociaciones de productores hablamos de ayudas en maquinaria tratamientos fitosanitarios análisis del suelo

avisos para plagas y enfermedades de riesgo semillas en definitiva el sector debe contar con un apoyo para garantizar que su producción

una estabilidad que es necesaria en el sector porque hablamos de los productores remolacheros alaveses unos buenos profesionales que trabajan las explotaciones bien equipadas con maquinarias y regadío

y realizan un gran esfuerzo por ser competitivos y rentables ese es su presente pero tenemos que hablar de su futuro el reto fundamental es mantener el cultivo y ayudar

a que sea lo más rentable posible teniendo en cuenta que en el norte de españa y por lo tanto también en álava

de costes respecto a los que se produce por nuestros competidores europeos nuestra producción es más cara unos ocho o diez euros

y la razón está en la mayor necesidad de riego de nuestras explotaciones la modificación de la ocm del azúcar la nueva pac el sistema de cuotas que finaliza el treinta de septiembre de dos mil diecisiete todas estas son amenazas sobre el sector que ya

si hace diez años había cuatrocientos explotaciones hoy hay ciento sesenta si hace diez años había tres mil hectáreas sembradas

el gobierno vasco debe garantizar la estabilidad del sector

utilizando la articulación que nos ofrece la pac utilizando tanto las ayudas asociadas

esto es lo referido a la parte económica y la repercusión de la misma pero buscamos otra cosa también buscamos la estabilidad de la población rural de nuestra comunidad que nuestros campos y pueblos sigan vivos

incertidumbres que rodean al sector y necesitan tiempo para mejorar en competitividad estas incertidumbres afectan al campo y a las fábricas azucareras y entre todos hay que encontrar el modo

se debe dar tiempo para que el plan sectorial de la remolacha dé sus frutos en mejoras a través de un mayor volumen de actividad

es de incertidumbre ya que parte de las ayudas que se han venido destinando tradicionalmente de apoyo al cultivo cesan por mandato europeo

y de precios que están teniendo los remolacheros hace necesario plantearnos a futuro para poder cambiar la situación actual

nos preocupa de forma extraordinaria las perspectivas de los mercados agrarios en la unión europea dos mil quince dos mil veinticinco

política azucarera de la unión europea de dos mil diecisiete podrá provocar el despegue de la producción

las industrias de bebidas y alimentación alternativa

alternativos y los consumidores parecen apuntarse a esa tendencia probablemente también con una confusión provocada por el mercado

o etiquetados como sin azúcar en todos estos datos

nos debemos preguntar las instituciones antes de cualquier cambio en el sistema actual es el efectivo que tendría una eliminación de cuotas

azucarero el efecto de la producción y como ya he apuntado

en ámbitos de consumo si contamos con precios más bajos desaparición de cuotas mayor producción de azúcar que puede llegar

y diecinueve millónes de toneladas en el dos mil veinticinco puede suponer un cinco o un seis por ciento más de producción de lo que se está produciendo

estos son los problemas busquemos las herramientas necesarias que ayuden al crecimiento sostenible de este sector remolachero y de nuestros productores

que hemos acordado porque debemos seguir trabajando y establecer nuevas líneas de actuación con el objetivo de lograr un sector remolachero competitivo estable y sostenible con un incremento de la rentabilidad y poder garantizar la continuidad del sector nada más y muchas gracias

bertatik bai eskerrik asko lo prescindible si breve casi mejor

casi seguro que no me lo quedo para mí y digo prescindible porque esta moción viene de origen de una interpelación de la señora lópez de ocariz a la consejera de desarrollo económico y competitividad señora arantza tapia

era casi absoluto si además hemos sido capaces de trasladar aquel acuerdo que tenían a una transacción de la mayoría de este parlamento

si además esa transacción que hemos pactado la acepta absolutamente y encantados el sector remolachero alavés si además mis compañeros de bancada me piden que ya es hora que están cansos si además

a quien felicito desde aquí y le obsequio con no alargar mucho el debate lo cual no quiere decir que el jueves que viene sí lo alarguemos porque ya no será su cumpleaños si además

está en el paroxismo de su creación pues casi mejor doy por defendida la transacción y

casi dejo de hablar porque hablo muchísimo al hablar muchísimo meto la pata mucho

y al herir sensibilidades luego tengo que pedir perdón y desde aquí lo hago sinceramente